perdone no esta funcionando el servicio de traducción y pensábamos que estábamos votamos la propuesta que teníamos transaccionada y no la enmienda del pnv

esa ya se votó antes que esa ya se votó en su momento

buenos días a todos gracias presidenta para quien no conozca el proyecto géminis que creo que hay más de uno en esta cámara que no lo conoce

dicen que fue concedido el dieciséis de septiembre de dos mil once y las pruebas de sísmica se llevaron a cabo el tercer y cuarto año a partir de la concesión

por tanto llamémosle proyecto géminis pero de lo que estamos hablando es del fracking y ante el proyecto géminis sorprende

sorprende el silencio del lehendakari y sorprende mucho estamos

y sobre su mesa hay una petición de opinión sobre este proyecto sobre el impacto de las pruebas sísmicas previas a la exploración del fracking y si en este parlamento hablamos de esto es porque desde una parte de la oposición pedimos explicaciones y proponemos un pronunciamiento

cada vez más notoria por parte del gobierno respecto a este tema ellos sabrán por qué lo ocultan y nos sorprende porque en un momento en el que la extracción de hidrocarburos

ilp cuya toma en consideración fue aprobada por unanimidad con una explicación cuanto menos rara por parte del gobierno

en debate y también por qué negarlo controvertido hubiera parecido lógico saber qué opina el gobierno al respecto cuál es su posición en este caso concreto que es diferente a otros proyectos y cuáles son o serán las aportaciones del gobierno vasco al ministerio competente

este gobierno que ya ha puesto en pista este y otros proyectos no hubieran dado ningún tipo de explicación porque hoy hablamos del proyecto géminis pero estamos hablando del fracking

por el clamoroso ruido hecho por el partido nacionalista vasco y por el entonces candidato en la campaña de las elecciones autonómicas que le llevaron a ajuria enea y leo literalmente el blog del señor urkullu a cuatro días de iniciarse la campaña electoral hace dos años

la postura de eaj pnv sobre la extracción de estas reservas energéticas es clara ni explotación ni exploración en mayúsculas con ninguna técnica

o llámese como se quiera si no garantiza el cumplimiento de la normativa medioambiental y si no respeta

era una posición absolutamente coherente con que un mes antes en plena precampaña su partido hubiese promovido una iniciativa legal en juntas generales con el único objetivo de prohibir el fracking

y de la que empezó a retractarse unos meses después hasta rechazarla ahora y esa posición era también coherente

tanto en ayuntamientos como en juntas en contra de cualquier actividad relacionada con el fracking todos somos presos de las hemerotecas de hecho no faltará quien me recuerde a mí misma

obrero español gobernaba en españa pero desde luego

tenemos complejos en admitir que esa fue una decisión equivocada

que se pueden seguir adoptando esta es reversible y que está en manos del país vasco aquí en euskadi poder darle la vuelta

nosotros dijimos y décimos que no podemos prohibir el fracking desde euskadi por falta de competencias y dijimos y décimos que no caben proyectos sin garantías medioambientales es lo que dijimos y lo que haremos con seguridad jurídica no apoyaremos una prohibición genérica a sabiendas de su ilegalidad y lo que pretendemos hoy y siempre

para poder proteger el medioambiente la salud de las personas y por qué no decirlo las arcas públicas porque en euskadi a diferencia del resto de españa algo de lo que nadie quiere hablar

dato que nos parece diferenciador y muy importante en el resto de españa quien quiere explotar el fracking lo hace con su propio dinero

estamos en el momento previo a legislar y aquí empezamos a retratarnos más exigencias más garantías y más control o más opacidad más silencio y más gasto opción del partido nacionalista vasco y de quien ahora quiere unirse a ellos salvándoles los papeles como siempre

y acabar dando la callada por respuesta no se puede reclamar lo que no está en manos de uno hacer como es prohibir y hacer dejación de la propia responsabilidad

y la competencia en manos del gobierno es decirle al gobierno de españa que quiere comprobar si las pruebas sísmicas tienen un impacto ambiental compatible con la normativa vasca

este parlamento mejor dicho algunos partidos políticos de este parlamento le pide al gobierno que se deje oír en el procedimiento abierto y que en coherencia con lo que estamos acordando

que regule la extracción de hidrocarburos se extremen todas las medidas de protección ambiental es lo que venimos repitiendo nada sin garantías ambientales y para las personas

con el uso de maquinaria pesada en zonas con distinto grado de protección y con el impacto

por la provocación de los movimientos de tierra por eso nos sorprende

la disyuntiva está en esperar que pase el tiempo corran los plazos y esconderse detrás de una declaración de impacto ambiental

y avala el partido popular con la maravillosa ley que aprobó el gobierno de españa u optar por una declaración de impacto ambiental estratégica cuyo nivel de control y exigencia

en las políticas planes y programas señorías

parece ser que todos coincidimos en las dudas los posibles peligros y sobre todo en la necesidad de precaución y sin embargo el tiempo hoy corre a nuestro favor porque

en frenar para tener todas las garantías pedimos información para que no existan vacíos intencionados por algunos reflexionamos sobre la posibilidad de la idoneidad del momento hay quienes disfrazan el debate con discursos técnicos teóricos y excusas competenciales muy recurrentes para el partido del gobierno porque para ellos competencias todas las que faltan pero las que tenemos mejor ni nombrarlas en este parlamento estamos trabajando en una ponencia

que coinciden una y otra vez en la necesidad de replantearnos el sistema y modelo energético actual es verdad que hay que trabajar reflexionar y sobre todo pactar

parece o al menos eso creíamos es alejarnos de combustibles fósiles de energías nucleares

es a energías limpias renovables de futuro con un protagonismo esencial del medio ambiente y alejadas del bolsillo de los de siempre el tiempo ha pasado y empieza

o discursos técnicos cargados de teoría pero lejos de la realidad política y en este caso ambiental del país el proyecto géminis es otro ejemplo más de la falta de transparencia falta de gestión y falta de cumplimiento de las competencias ustedes igual que nosotros saben que la declaración de impacto ambiental estratégica es más garantista

y marcaría un precedente que determinaría decisiones en proyectos ambientales ilegales futuros por tanto tenemos dos opciones seguir contando cuentos para no dormir o hacer política de verdad con el tema del fracking nosotros lo tenemos claro

en el que se recogen los dos puntos que entendemos que pueden salvaguardar el tema la declaración de impacto ambiental estratégica por mucho que se empeñen ustedes en decir

es mucho más exigente y tiene muchas más garantías medioambientales para cualquier proyecto que está en marcha lo que está claro es que hay dos posibilidades seguir facilitándole al pnv que lleve a cabo estos proyectos sin decir nada

o empezar a poner frenos con norma jurídica que exija las mejores garantías medioambientales por tanto

la enmienda transaccional firmada con eh bildu porque creemos que es más garantista y seguramente a partir de ahora llegarán aquí todas las intervenciones en las que

lo equivocados que somos o en el tiempo que no es el momento de hablar de esto

o que en esa declaración de impacto ambiental estratégica algunos hemos visto un carácter que parece que no tiene

gomendio horrek antes de conceder una autorización para una exploración y o producción de hidrocarburos y esto es importante porque diferencia la exploración que es en el trámite donde nos encontramos ahora en el caso de géminis

que puedan dar lugar a la aplicación de la fracturación hidráulica los estados miembros deben preparar una evaluación ambiental estratégica para prevenir gestionar y reducir los impactos y los riesgos para la salud humana y el medio ambiente muy clarito lo dice evaluación ambiental

de medio ambiente no quiere hacer en el caso de géminis y justo lo que nos tememos la consejería de medio ambiente no le ha propuesto al ministerio estatal que lo haga en el caso del permiso

buenos días gracias señora presidenta señor lehendakari señores consejeros

una iniciativa que hace referencia a la tramitación de la solicitud de permiso para los trabajos

en el permiso de investigación para hidrocarburos denominado

recordar que este permiso de investigación fue autorizado por decreto de gobierno central en septiembre del dos mil once

ya se aportaba el documento ambiental la empresa promotora

presenta ante la dirección de minas la solicitud para iniciar los trabajos de sísmica contemplados ya en el permiso de autorización esta dirección envía el documento a la subdirección general de evaluación ambiental para que inicie la tramitación ambiental esta dirección considera que el documento ambiental presentado por la empresa no es suficiente

ampliación por eso el expediente tiene una adenda sobre impactos de red natura dos mil y se inicia el trámite que en primer lugar una consulta a las administraciones afectadas en este caso las administraciones afectadas y consultadas son diversas direcciones del gobierno vasco dirección de medio ambiente planificación territorial dirección de energía y minas dirección de patrimonio y ura y además son consultados

esta fase de consulta tiene un plazo de tres meses que finaliza el veintisiete de enero de dos mil quince esta es la fase en la que nos encontramos en este

el grupo popular presenta una enmienda y qué décimos en el grupo popular primero

se informe al órgano sustantivo de las condiciones de los limites

que consideren necesarias para garantizar la máxima protección ambiental mediante la aplicación de estrictos criterios técnicos segundo donde la iniciativa dice que instemos al gobierno vasco para que asesore a los ayuntamientos

que es competencia de las diputaciones el asesorar a los ayuntamientos no del gobierno vasco no nos vamos a saltar la ley de territorios históricos

se ha ido desarrollando y que reitera una y otra vez que esto es una competencia de las diputaciones

que asesore a los ayuntamientos son veintiocho ayuntamientos muchos de ellos

elaborar esas alegaciones y por lo tanto le décimos que ponga a su disposición a aquellos ayuntamientos que así lo soliciten los medios jurídicos y técnicos para que puedan presentar las alegaciones en la consulta que está abierta en este momento

no quiere presentar cuando aún le queda un mes para presentar las alegaciones me parece ya que cualquier resultado para ustedes es igual no

como el gobierno vasco presente me gustaría saber cuántos ayuntamientos de los que ustedes gobiernan de esos veintiocho han presentado alegaciones me gustaría saber

que aún queda plazo decía la portavoz del grupo

que lo que piden ustedes son las máximas medidas señora rojo nosotros pedimos aquellas medidas límites y condiciones

y además décimos que esto sea mediante la aplicación de estrictos criterios técnicos yo tanto al grupo socialista como a eh bildu les quería decir si es posible

pudiéramos tener un debate sosegado sosegado y

que es de energía de alternativas del tránsito de la energía convencional

podemos hablar de eso pero es que ustedes aquí están mirando en mayo están mirando en el mes de mayo y no ven más

señores vamos a hacer un debate sosegado este fin de semana podíamos leer un artículo de un especialista en minas que decía bueno no se puede hacer un debate sosegado

haya ustedes nosotros no nos vamos a enredar en su barro porque no nos interesa y porque no aporta nada decir que el ministerio quiere hacer un tipo de evaluación u otra

el catorce de octubre se hicieron públicas tres evaluaciones de impacto ambiental para permisos prácticamente parecidos a este dos

la evaluación de impacto ambiental fue favorable uno fue negativo señores creo que ustedes presuponen

del que no tienen ni idea aquí todos los días se reciben solicitudes de evaluación de impacto ambiental por permisos muy similares

en el año dos mil catorce o en el dos mil trece pero qué pasa este es el único punto en esta comunidad autónoma donde todo el mundo lo hace mal solo ustedes están en el acierto

los demás también tenemos que cambiar de criterio oiga perdone ustedes hagan el pino el trompo lo que quieran nosotros estamos manteniendo un criterio y creemos que nos asiste la razón y estamos pidiendo lo que dice la directiva europea porque la directiva europea en el punto tres habla

planificación estratégica y evaluación de impacto ambiental ustedes han cogido una frase del contexto

lo han unido y lo han dirigido a su criterio o a su entender porque su interpretación no es la mejor interpretación

nadie lo interpreta como lo han dicho ustedes nadie ustedes se han metido cómo me diferencio del resto porque ustedes no quieren acuerdo ustedes quieren

nosotros seguiremos en nuestra responsabilidad exigiendo que las evaluaciones de impacto ambiental contemplen todos los límites todas las condiciones las más exigentes para garantizar la máxima protección ambiental y además lo que décimos mediante la aplicación

no se inventen añadidos no interpreten

la directiva europea en el punto tres dice claramente planificación estratégica y evaluación de impacto ambiental

que en este asunto como en todos pero en este más me parece una auténtica irresponsabilidad

ayer mismo en la comisión de medio ambiente y política territorial asistimos a otro capítulo de esta mista estrategia

este proyecto géminis señorías nos corresponde a los parlamentarios ser precisos identificar la naturaleza de las cuestiones a debate para discutir sobre los problemas concretos

para no perdernos en cuestiones grandiosas y evidentemente todo ello sin olvidar los principios generales la esencia de las cosas en la cuestión que hoy nos ha traído el grupo socialista este grupo realiza claramente labores de vientre o madre de alquiler del grupo bildu y décimos que realiza labores

que hoy vemos en el pleno es copia literal de otra presentada por bildu en comisión hace quince días y que fue posteriormente retirada por el mismo grupo

por los ministerios de agricultura e industria concretamente en el procedimiento de evaluación de

a la autorización de los trabajos de sísmica en el seno de un proyecto de investigación de hidrocarburos la campaña sísmica tiene por objeto la investigación profunda del subsuelo que proporcione datos útiles sobre las características de los hidrocarburos que pudieran existir por tanto para ser más exactos en este caso se trata de una actuación concreta que se inserta en un proyecto más amplio digamos que es una parte del mismo la proponente

literalmente que resulta llamativo que esta consulta se realice al hilo de la campaña sísmica para esta parte es un error evidente porque lo que habría que evaluar sería el permiso de investigación en su totalidad y no en esta campaña sísmica en concreto por cierto la proponente habla de esta parte refiriéndose supongo que al grupo socialista pero no nos dice cuál es la otra parte

o quién y todo esto se ha afirma de un proyecto autorizado por el consejo de ministros aprobado

que lleva la antefirma del señor miguel sebastián que creo que pertenece al mismo partido político que la señora rojo

el programa de investigación comprometido consistente en que en su tercer y cuarto año de vigencia realizará una campaña sísmica como paso previo a un estudio de viabilidad técnica y económica de la perforación de un pozo de exploración y posteriormente si fuere viable se realiza el estudio de impacto ambiental del sondeo esto es lo que dice el real decreto aprobado por el gobierno socialista

otorgó esa autorización el gobierno de euskadi se hallaba en manos del partido socialista por eso décimos que se trata de un ejercicio político en el que se practica el disfraz y la máscara

sin haberla realizado previamente cuando pudieron haberla exigido ahora y aquí nos dicen que fue un error señora rojo lo de hoy es un error o no es un error que credibilidad tiene

se solicita que el departamento haga llegar su opinión al órgano ambiental competente dentro del trámite de consultas en el procedimiento de evaluación ambiental pues bien como ya respondió la señora consejera a una pregunta oral sobre este mismo asunto realizada por el señor maeztu la pasada semana

dentro del plazo legalmente establecido mediante la remisión de un informe al ministerio de agricultura y medio ambiente por eso hemos presentado una enmienda en la que proponíamos y proponemos

y la biodiversidad que pudieran resultar afectadas

tanto el grupo proponente como bildu cometen un error grave al exigir una evaluación ambiental estratégica a las labores de la campaña sísmica que se pretende realizar

se realiza sobre planes y programas tanto la evaluación ambiental

que les leo literalmente dice así conjunto de estrategias directrices y propuestas destinadas

no ejecutables directamente si no a través de su desarrollo por medio de uno o varios proyectos es decir exige dos requisitos acumulativos

y que no sean ejecutables directamente si no que necesiten para su desarrollo de un conjunto de proyectos nosotros entendemos que lo que se pretende con la campaña sísmica encaja mejor en la definición de proyecto una actuación que consista

o cualquier intervención en el medio natural o en el paisaje por eso nosotros entendemos que con la realización de esta campaña sísmica

no nos encontramos ante un plan o programa finalmente decir que hemos alcanzado un acuerdo con el grupo popular que ya ha sido explicado por la señora lópez de ocariz y que en aplicación del principio de economía procesal y para no

y por eso solicitamos el apoyo de esta cámara a la vista de las exposiciones habidas del representante del grupo upyd que es el único que queda por definirse besterik ez eskerrik asko

a todas y a todos señor lehendakari el permiso de investigación de hidrocarburos denominado géminis que hoy nos ocupa fue concedido

en dos mil once junto a otros diecisiete más que el partido socialista obrero español concedió ese mismo año un permiso fue concedido por el partido popular en cantabria puesto que solo competía a la comunidad autónoma en ese caso

según el artículo tres de la ley treinta y cuatro barra mil novecientos noventa y ocho de siete de octubre del sector de hidrocarburos la concesión de estos permisos cuando afecten a más de una comunidad autónoma

por tanto la legislación vigente otorga la capacidad de conceder permisos de hidrocarburos al gobierno central siempre que afecten a dos o más comunidades autónomas o cuando estén situados en aguas territoriales españolas

áreas de tierra y mar en euskadi concretamente en la provincia de bizkaia por tanto las decisiones le corresponden al estado español consulta de evaluación de impacto ambiental cumple lo establecido por la ley el proyecto constaría de varias fases una vez que se ha completado la primera fase

en la que la empresa ha realizado las inversiones y los estudios a los que se comprometió se pasa a la segunda fase en la que el estado debe autorizar los estudios de sísmica terrestre y en su caso un sondeo de exploración

en donde se realizaría el sondeo de exploración el estado por tanto cumple

a los organismos competentes y a todos los interesados que podrán presentar las alegaciones

como se quiere hablar del fraking hablemos pues del fraking como ya manifestamos hace unos días cuando se presentó la iniciativa legislativa popular referida al fraking estamos en contra de prohibir la exploración

en euskadi es algo que claramente propone alguna formación política en euskadi posición legítima y respetable pero que nosotros no consideramos apropiada toda fuente energética trae consigo inconvenientes y lo que realmente necesario es minimizar los riesgos

de energía pueda conllevar tenemos un claro problema energético en españa

el cambio de modelo económico que necesitamos los hidrocarburos son hoy por hoy

y caro del que no podemos prescindir al menos por el momento el cuarenta y seis por ciento de la energía básica que consumimos procede de los hidrocarburos y esta es una realidad que debemos afrontar como ya se ha comentado tanto aquí y como a nivel nacional y como ya propuso el parlamento

compartimos las técnicas de extracción deben prohibirse cuando supongan un riesgo evidente para los ciudadanos y por lo tanto cuando se lleven a cabo deben realizarse con todas las garantías y hacerlo bien no solo es deseable sino también perfectamente

en distintas partes del mundo y se ha realizado correctamente es necesario que exista una mayor y más exigente regulación pero esto no puede suponer echar por tierra proyectos que fueron concedidos en el pasado y que cumplen con la legalidad quiero

todas las fuentes energéticas tienen inconvenientes y obviamente también el fraking de lo que se trata no es de prohibir totalmente

sino de tal y como propuso el parlamento europeo que el fraking se prohíba allí donde su uso implique un riesgo elevado evidente cierto perfectamente demostrado se trata por lo tanto de que la regulación sea exigente por ello en su momento presentamos

no de ley en el congreso de los diputados en la que señalábamos algunas cosas como las siguientes el coste de la energía es uno de los factores fundamentales de la competitividad económica

nuestra extrema dependencia energética hace imprescindible la exploración investigación y valoración realista de nuestros recursos en hidrocarburos y la viabilidad técnica económica y medioambiental de su explotación

tales como el gas obtenido mediante fraking o la extracción de metano en capas

pueden producir daños medioambientales severos si no se realizan con suficiente garantías preventivas sin embargo la solución no es prohibir ni impedir la investigación de sus posibilidades y consecuencias sino establecer criterios legales rigurosos para autorizar la exploración y explotación

mínimo y reparable no existen fuentes de energía que no tengan algún tipo de impacto medioambiental negativo incluidas las fuentes energéticas conocidas como renovables por lo que la misión de la política energética es escoger aquellas fuentes disponibles más convenientes en términos de eficiencia coste

y sostenibilidad regulando y evaluando constantemente las condiciones y requisitos de investigación exploración y en su caso

la regulación legal por tanto resulta urgente de ahí aquella iniciativa planteada por upyd el camino no debe ser la prohibición

adecuada que nos permita realizar las extracciones de los recursos que son totalmente necesarios en condiciones de seguridad despejando la vía hacia el cambio de modelo económico que necesitamos volviendo a la proposición no de ley del grupo

nos sorprende el hecho de que este grupo en su justificación afirme que hay algún tipo de error y que hay que evaluar el proyecto completo en nuestra opinión

y el gobierno vasco debe realizar lo que le corresponde en cumplimiento de lo que la ley dice y es también lo que nosotros obviamente le exigimos efectivamente pensamos ya se hadicho que el partido socialista de euskadi está tratando de adelantar plazos adelantar y hacer ver su posición contraria al fracking creo que este es el último objetivo de esta iniciativa planteada por el grupo socialista y lo mismo o parecido valdría para eh bildu vistas las enmiendas transaccionales y escuchados los discursos de los diferentes grupos nos parece más apropiada la transaccional firmada entre el grupo popular y el grupo nacionalistas vascos se insta al gobierno a que en el periodo de consultas del proyecto de campaña sísmica terrestre del permiso de investigación de hidrocarburos géminis informe de las condiciones y medidas que considere necesarias para garantizar la máxima protección ambiental mediante la aplicación de estrictos criterios técnicos esto a nosotros nos parece correcto esto es lo que se le pide al gobierno y es lo que nosotros vamos a apoyar con nuestro voto

gracias otra vez presidenta señor maneiro ya sabíamos lo que usted iba a hacer porque en realidad aquí ya nada es casualidad ustedes

junto con el partido popular y con los nacionalistas vascos el quince de febrero de este año ya votaron a favor del fracking en el congreso de los diputados por lo tanto para una vez que no cambian de opinión aquí no nos ha sorprendido el voto le diré por empezar el orden señora lópez de ocariz

lo voy a intentar pero es que cada uno es como es es que yo vengo aquí y depende de lo que oigo lo sosegado va en el fondo espero que no en el tono

usted nos deja claro que usted ha venido aquí en este tema y creo que hoy es el punto de partida de lo que viene a defender al gobierno vasco de algo que podían tener un problema y que ustedes junto con el señor maneiro se lo van a poner facilísimo pero facilísimo estoy hablando señor erkoreka por tanto

punto de empezar a debatir la ilp y el partido popular ya sabemos que le va a facilitar

para poner en pista el fracking con las menores garantías más que pensando en quien se va a beneficiar que desde luego no va a ser ni el medio ambiente vasco ni la ciudadanía vasca

ya cambió el partido popular en españa lo que quería cambiar para favorecer el fracking y

es por qué usted si cree que lo que dice es la definición de declaración de impacto ambiental estratégica por qué no quiere que aparezca el concepto eso es lo que quiero que me explique lo que usted dice lo tengo clarísimo y usted sabe cuál era la posición de bildu y el partido socialista de euskadi

y desde luego usted habla del mes de mayo si los que tienen un problema en mayo son ustedes

y ustedes aquí defienden la contraria si el grupo nacionalista tiene el mismo problema

porque son los que tienen la incoherencia dentro con el tema del fracking y señor aldaiturriaga

no le voy a explicar por qué he sido yo la que he presentado la iniciativa del señor maeztu

y lo que pasa fuera de esta tribuna no se cuenta es cortesía parlamentaria

el motivo por el que yo presento la iniciativa de bildu por lo tanto menos faltar y un poco más preguntar porque usted sabe que no tengo ningún problema en haberle explicado cuál era el motivo por el que yo presento la iniciativa de bildu de todas formas quien está en la mesa en su partido

el señor san sebastián no es del partido socialista obrero español

pero no es ahora le voy a poner unos ejemplos

y dijo lo que dijo respecto al fracking el señor ramiro gonzález es el partido nacionalista vasco

lehendakari de euskadi y dijo lo que dijo respecto al fracking

y todos dijeron el pnv en contra del fracking no solo explotación sino exploración sí señor urkullu porque al final lo que uno escribe queda lo que uno escribe queda señor urkullu

para convencer se falta a la verdad por no decir otra palabra y en el fondo todos somos presos de las hemerotecas natalia rojo dijo lo que dijo

en decir que nos equivocamos y cada vez más informes más expertos más dudas más preocupación

mienten y qué es lo peor que se han encontrado unos socios que como está en el partido popular en las antípodas

pasa lo que pasa y señor maneiro a usted qué quiere que le diga pues no me sorprende usted upyd pro nuclear

pro energía es verdad a coste de lo que sea les da igual la contaminación

son partidos de derechas el bolsillo las empresas algunos

mentira ustedes faltan a la verdad y el proyecto géminis nadie está pretendiendo decir que se intente cambiar la ley para hacer no sé qué que no

que mande o a la señora oregi porque están mezcladas y no se ponen muy de acuerdo que manden al ministerio

ambientales es lo único que pedimos no pedimos que se invente algo para frenar nada pedimos que se proteja el medio ambiente porque señores del pnv

contra el fracking y la política suya señor urkullu no es de pancarta contra el fracking

y dejando al señor rajoy que campe a sus anchas las competencias sí

hay que ejercerlas porque el país es de todos y no solo de las empresas que ustedes quieren favorecer porque le recuerdo que el dinero de los vascos es de todos de los nacionalistas y de los no nacionalistas y somos la única comunidad autónoma

gran diferencia respecto al resto de españa de eso es de lo que tiene que dar explicaciones ahora ha habido una campaña electoral a ver lo que dice el señor ramiro gonzález a ver lo que dice el señor

pero dejen de mentir eskerrik asko rojo andrea

ni explotación si no se garantiza el cumplimiento de la normativa medioambiental hori zen bere esaldia bere osotasunean veamos lo que dice la normativa medioambiental

una evaluación ordinaria solo regula esto el impacto directo de un pozo sobre el medio ambiente en este caso las balsas con los residuos químicos que salen del pozo el impacto que puede tener todos estos camiones todos estos vehículos incluso lo que no se ve que es

esto es una evaluación de impacto ambiental ordinaria y lo que evaluaría pero esto no es el fracking el fracking es esto

señora aldaiturriaga como usted ha dicho el fracking necesita del desarrollo

para hacer una explotación de factura hidráulica esto es lo que hay que medir esto es lo que hay que medir y esto lo mide una evaluación de impacto ambiental estratégica no una

tenemos que saber antes de empezar a poner en marcha los permisos si nos podemos permitir medioambientalmente económicamente y socialmente esto y eso lo mide

y no lo dice euskal herria bildu en el día de hoy esto lo dice la comisión europea y me gustaría también que con argumentos me digan

en la recomendación de la comisión el veintidós de enero relativa a unos principios mínimos para la exploración y producción de hidrocarburos como el gas de esquisto utilizando la fracturación hidráulica

antes de conceder una autorización para una exploración y en este caso estamos en el tema de géminis y o producción de hidrocarburos que pueda dar lugar a la aplicación de la fracturación hidráulica los estados miembros deben preparar una evaluación ambiental estratégica

si es sostenible y nos podemos permitir una explotación de estas características orduan hori da galdera prozedura martxan dago géminis kasuan

señora rojo bueno después del ejemplo que ustedes nos han dado aquí del estilo de formación

pues poco que decir verdad su credibilidad tiene su postura

qué credibilidad le podemos dar no si la cambia cada tres años en este caso en otros en menos

y cómo se permite calificar la credibilidad de los demás con el ejemplo que usted nos da de verdad nosotros y creo que estamos ajustándonos a la realidad

que es del dos mil once ustedes cuando les interesa confunden la parte con el todo para luego hablar del todo en lugar de la parte el permiso

el permiso en el artículo dos habla de los trabajos mínimos dice que en el tercer y cuarto año se desarrollará la campaña sísmica el quinto año y el sexto

lo tienen ustedes marcado en el decreto que autorizaron su gobierno señora rojo su gobierno pero es que además hablan más habla de las medidas de protección

ese decreto y dice que se establecerán según se determine en el texto refundido de la ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos

y este decreto es quien regula este permiso no hay otras

no por nada sino porque ustedes así lo determinaron rojo y esta es la realidad habla de autorización de trabajos específicos y lo definen ustedes qué están pidiendo ahora ahora qué pide señora rojo nos quiere hacer responsables a los demás grupos de sus contradicciones señora rojo no sé si le interesa este tema de verdad le interesa señora rojo le interesa

señora rojo está claro que es que a usted esto no le importa

y lo más duro es que estemos hablando de un tema trascendental que a usted no le importa nada porque mañana puede cambiarlo otra vez

estamos en un tránsito hasta mayo luego ya veremos lo que hace usted y yo quiero recordarle

que no nos sorprende ha hecho otra vez un ejercicio aquí

claro es que ustedes trabajan con unos límites muy cortos

usted va a la foto de mañana no va más allá ese es su futuro nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz

eskerrik asko mahaiburu andrea en primer lugar agradecer al señor maneiro el apoyo que va a prestar a la enmienda transaccional pactada con el grupo popular

yo cuando hablaba de vientre de alquiler me refería porque simplemente he constatado el documento que presentó bildu hace quince días con el que han presentado ustedes que es que es copia literal inclusive hasta en los errores

al respecto simplemente basta con cotejar los documentos presentados en esta cámara

respecto a la postura del lehendakari y del partido nacionalista vasco en esta cuestión

dejado infinidad de veces claro y lo vamos a seguir haciendo una vez más quiero

los recursos naturales que puedan existir en euskadi en el subsuelo pero no a la explotación y a la exploración sin las debidas garantías ambientales eso en resumidas cuentas es la postura de nuestro grupo en todas las instancias

un poco más pequeña o menos llamativa que la de hace quince días con el fracking aunque no es el motivo de la

a mí simplemente me viene a la cabeza un refrán proverbio de un clásico de un

no va a decir más que grandes tonterías tengo la impresión señorías más bien la constatación de que a ustedes bildu y el partido socialista no les interesa lo más mínimo la protección de los valores ambientales de las zonas afectadas

para oponerse a otros proyectos a otros debates

la negación por sistema a evaluar la posible existencia de recursos naturales

ustedes utilizan además la cuestión ambiental para buscar un enfrentamiento entre instituciones

bizkaia con el gobierno de españa y con los municipios como ya he dicho anteriormente y señorías ni para una ni para la otra

ni para el enfrentamiento entre instituciones sobre este asunto van a contar con nuestro apoyo

respecto a la recomendación de la comisión europea que me ha requerido el señor maeztu

los textos hay que comenzarlos por el principio porque sino ocurre lo mismo que cuando el

de sentido en este sentido

los estados miembros tienen derecho a determinar las condiciones de explotación de los recursos energéticos siempre y cuando respeten la necesidad de preservar proteger y mejorar la calidad del medio ambiente en el primer

considerando y en la primera resolución del final y ojo que dice que

a los estados miembros que deseen realizar actividades de exploración y producción de hidrocarburos mediante la fractura hidráulica de alto volumen por tanto lo que le decía señor maeztu que hay que comenzar los documentos por el principio

porque si no ocurre lo que ocurre que nos estamos metidos en un lio en el que a rio revuelto ganancias pescadores y ustedes en ese sentido se mueven bastante bien

hablando de conceder una autorización para una exploración y o producción de hidrocarburos ahora estamos hablando de un proyecto de investigación sísmica que no está incluido en ninguno de los anexos de la ley de evaluación ambiental por tanto en principio y según algunas interpelaciones ni siquiera está

al procedimiento de evaluación ambiental los trabajos de la campaña sísmica

ustedes demandan que se efectúe una evaluación ambiental estratégica y yo les voy a manifestar una perogrullada

obviamente debe existir ese plan o ese programa y yo les pregunto dónde está

qué administración lo ha elaborado o lo ha aprobado aún más qué plan va a realizar la administración si no se dispone de la información previa necesaria para elaborarlo para esto precisamente para obtener información es para lo que se realiza la campaña sísmica lo

en este asunto ponen el carro delante de los bueyes besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

señora rojo le voy a pedir encarecidamente un favor que cada vez que intervenga especialmente en las réplicas no grite tanto porque ciertamente molesta y no por mucho gritar ni elevar el tono de la voz uno tiene más la razón al revés

se le ha visto en la cara cuando yo he anunciado el voto favorable a la transaccional firmada entre el grupo popular y el grupo nacionalistas vascos usted en lugar de ponerse triste porque iba a perder la votación

usted ha venido aquí a lanzar soflamas a tratar de

y la derecha ese discurso no se lo cree absolutamente nadie yo he venido aquí con la disposición de escuchar a los distintos portavoces para comprobar si efectivamente me convencían más unos u otros y los argumentos explicados por los representantes del partido popular

pues lógicamente me han animado finalmente a votar a favor de esa

yo he intentado defender una serie de principios e ideas con mi intervención nosotros no vamos a votar a favor del fracking que es lo que usted quiere hoy vender

al presentar esta iniciativa he intentado hacer un discurso serio un discurso riguroso pero parece ser que la izquierda orgánica y tradicional a la que usted pertenece pues no le interesa en absoluto este tipo de discursos que no efectivamente que no todo es blanco o negro y que esta política vieja y antigua ha pasado realmente a la historia y que ya no se la cree absolutamente nadie yo he dicho que todas las fuentes energéticas tienen inconvenientes

sino de que el fracking se prohíba allí donde su uso implique un riesgo evidente y cierto he dicho que no existen fuentes de energía que no tengan algún tipo de impacto medioambiental negativo incluidas las fuentes energéticas conocidas como renovables por lo que la misión de la política energética y este es un tema muy serio es escoger aquellas fuente disponibles más convenientes en términos de eficiencia coste

lo otro es el pensamiento mágico que no soluciona los problemas de la ciudadanía

argumentos y hablar con seriedad a la ciudadanía cuál es la alternativa energética que ustedes proponen si dejamos aparte las soflamas

por lo tanto este debate exige rigor yo he dicho que el camino no debe ser la prohibición la regulación adecuada y he dicho que la solución no es prohibir el fracking ni impedir la investigación de sus posibilidades y consecuencias sino establecer criterios legales rigurosos para utilizar la exploración y explotación con un daño medioambiental mínimo y reparable a usted esto le parece de derechas qué discurso más viejo y qué discurso más antiguo

que la corrupción política es de izquierdas debe ser que la política fiscal

muy de izquierdas debe ser que la defensa del fracking que realizó el lehendakari anterior era muy de izquierdas debe ser que defender privilegios económicos de algunos

o incluso que sea muy de izquierdas incrementar los beneficios a la iglesia católica que puso en marcha el gobierno socialista todo eso debe ser

allá usted yo creo que lo que usted venía aquí a decir era que

somos enemigos públicos número uno y esto es

y yo creo que nadie en la ciudadanía se lo cree es un discurso viejo y antiguo yo prefiero hacer un debate más serio más riguroso

de una interpelación en la que se preguntaba el consejero hace tres semanas en esta tribuna por nuestra posición sobre el futuro del onkologiko

hacer caso omiso a la oposición posición manifestada por este grupo en este parlamento hace veinte meses con el voto favorable de mi grupo pidiendo la integración de este prestigioso y necesario centro en el sistema público

ya sabemos desde luego que el consejero se toma los acuerdos de esta cámara a beneficio de inventario y todavía

haber escuchado el acuerdo parlamentario plenario decía tengo dudas de si ustedes quieren ver integrado el centro o cerrado pues bien presentamos esta moción para que el consejero no tenga dudas sobre la posición del grupo parlamentario socialista

esto es lo que proponemos el parlamento vasco reitera el mandato del pleno del siete de marzo de dos mil trece para integrar el instituto onkologiko en la red pública de osakidetza a fin de evitar

monográfico desde que nació en mil novecientos veintiocho siempre fue un instituto anticanceroso siempre fue de un tratamiento para el cáncer

de otras empresas privadas en clara competencia desleal con otras iniciativas valiéndose de la financiación pública que le otorga el convenio

despeje todas las dudas que decía tener el representante del gobierno esas que mezcló con otras cuestiones como presencia de socialistas en el patronato y si se decía o se proponía esto o lo otro haciendo gala de que

a pesar de llevar dos años gobernando pero por si no estaba claro mire en primer lugar queremos que lo oncológico de donosti se integre en la red pública vasca primero

porque creemos que es la garantía de presente y de futuro y además por la garantía también de servicio sanitario prestado a la población guipuzcoana ambas cosas son francamente lo que nos mueven a plantear

en la red pública y lo hacemos con el mismo argumento que en su día respaldamos la integración de basurto en bizkaia o de el alto deba porque lo que fue posible para basurto

para el oncológico y gipuzkoa cuál es la razón decía el señor consejero

que fuera a tener un mejor futuro sin embargo si miramos a basurto cómo estaba cuando era privado y dependía de los patronos fundadores y cómo está hoy veinte años después de estar integrado en la red pública y coincidirán conmigo

innovación rehabilitación equipamiento atención sanitaria garantía para los trabajadores es decir ha mejorado

aquel centro cuya vocación es pública aunque históricamente haya sido privado cuando su función fundamental es pública debe de tener la posibilidad de entrar a la pública

no lo consideramos una empresa privada más que deba de seguir su curso y en función de qué ocurre con el mercado sanitario

y que por eso al igual que basurto merece ser tratado como basurto

el origen y la historia privada de determinadas instituciones son eso historia pero cuando lo que se presta es un servicio público que se financia con recursos públicos

por el servicio que prestan a determinada comunidad la integración plena en la red pública es la mejor garantía para su mantenimiento no es para cerrarlo

para que siga prestando ese servicio dados los ejemplos que le hemos comentado no entendemos porque la obcecación de este gobierno ante acuerdos ya mayoritariamente parlamentarios

el segundo motivo por el que solicitamos que el onkologikoa pase a la red pública es que no queremos

y funciona con recursos públicos aunque se gestione de forma privada pueda ser utilizado como puerta de entrada para otros intereses legítimos pero privados porque estos intereses

desvirtúan el carácter monográfico que todos defendemos para este centro como digo

mil novecientos veintiocho intereses privados

generan una competencia desleal con otras empresas privadas que para su supervivencia acuden a sus propios recursos bien absorciones

o bien cierres incluso en definitiva termino integración en la red pública defensa del carácter monográfico para tratamiento oncológicos

sin perjudicar otros intereses tres veces explicado en cuatro minutos

se le hayan disipado las dudas o si cualquier otro miembro del gobierno tiene dudas sobre la posición del partido socialista y del grupo parlamentario socialista queden bien claras

socialista la que yo acabo de expresar en nombre de mi grupo con esta duda que no fue objeto de la interpelación ni tampoco es objeto de la moción nos quedamos ahora a la espera de que el consejero despeje las suyas porque motivo de la interpelación y seguimos sin saber si de forma directa o indirecta el consejero ha dado el visto bueno

de locales del onkologikoa a una empresa privada con fines distintos del diagnóstico y tratamiento del cáncer es decir

seguimos sin saber si hay una empresa favorecida y que esta sea la misma

del consejero el responsable del área de salud y es responsabilidad del gobierno aclararlo porque el consejero en lugar de aclarar

y de nuevo cuando finalizó el pleno se dirigió al escaño para volver a reprochar la actitud de quien habla en fin digo claro lo que hay

a nadie de nada hay una solicitud de aclaración que para eso son las interpelaciones para indagar sobre los motivos o propósitos de la conducta del ejecutivo

según dice literalmente nuestro reglamento e intentando indagar sobre los propósitos de una decisión en la que participa el departamento de salud el consejero acusa al interpelante se enfada no contesta y lo peor de todo deja en el aire una sospecha y desde luego contradice varios artículos

de su propio gobierno por eso le instamos al gobierno a que impulse el cumplimiento del código ético sobre todo en los artículos cinco punto dos punto uno

punto tres y punto cuatro aquellos que se refieren a la imparcialidad y objetividad a la transparencia del gobierno abierto y el último el

sobre honestidad y desinterés subjetivo

cualquier interés que pueda obstruir sus funciones lo que afecta a cualquier incidencia por mínima que sea y deben alejar cualquier sospecha o duda

que la adopta a sus familiares conocidos o amistades o pueda en su caso estar incluida por intereses particulares de cualquier tipo y ya omito las referidas al debido respeto a otros cargos públicos

y ya se lo dijimos no vamos a consentir ni por aproximación

de que intereses privados son defendidos con recursos públicos con el anterior consejero nacionalista del pnv y el tema de la privatización de las listas de espera

y por pedirle aclaraciones se permitió sugerir que preguntemos por los contratos y por las derivaciones preguntas que el departamento sabe bien ya se van haciendo pero lo que nos importa hoy es que quede claro

queremos integrar a un centro de referencia para diagnosticar y tratar el cáncer

siga siendo oncológico financiado con recursos públicos aunque su origen fuera mixto

del esfuerzo de los guipuzcoanos a través del ahorro que luego se plasmó en la obra social de la kutxa siempre ha sido financiado con el ahorro de los guipuzcoanos

oncológico siempre ha atendido públicamente a todos los guipuzcoanos y queremos que siga así que se integre en la red pública que es la que garantiza ese presente y ese futuro que deseamos para el desarrollo oncológico en gipuzkoa queremos que se haga así por nuestra convicción en el servicio público como décimos

y porque queremos cerrar posibilidades que en nuestro

se cuelen aires privados los socialistas reconocemos no obstante la existencia de la concertación claro que sí reconocemos la existencia de importantes empresas sanitarias que prestan una función complementaria cuando la red pública no llega pero las empresas de gestión privada

cuando esto ocurre así cuando su sostenimiento es dinero público es con dinero público deben de ser en la red pública para que la planificación de los servicios la gestión de los servicios

ya que el sostenimiento lo es a través de los servicios públicos sea también de responsabilidad pública eso dijimos hace veinte meses eso

y eso defendemos hoy por si no había quedado claro

andrea lehendakaria sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi el oncológico desempeña un papel fundamental en la investigación

tratamiento y prevención del cáncer y es un centro monográfico con dedicación exclusiva a la oncología y en ese sentido constituye un claro

y con un equipo humano formado por excelentes profesionales

prebentzioan diagnostikoan eta tratamenduan erreferentzia bat da el oncológico es propiedad de kutxa lo asumió como obra social en el año mil novecientos cincuenta y dos y se convirtió en el año dos mil diez en fundación la fundación onkologikoa una fundación sin ánimo de lucro cuya actividad se limita a tareas

público cumple por tanto una función pública aunque su titularidad no sea pública desde hace más de veinte años forma ininterrumpida tiene suscrito un acuerdo de colaboración con el departamento de sanidad

se configura en función de esos acuerdos su papel dentro de la red sanitaria de euskadi el ochenta por ciento de su financiación

en virtud del cual se hace cargo de la atención de los pacientes que se derivan

y de otros lugares de euskadi también atiende a pacientes procedentes de seguros privados y a propios particulares

el inmenso servicio que ha prestado y sigue prestando a la población guipuzcoana y a la sociedad vasca así como tener en cuenta el reconocimiento que tiene

duen errekonozimendua el partido popular quiere garantizar el futuro del oncológico y no creemos que integrar el oncológico

son instituciones absolutamente complementarias porque ambas tienen una amplia cartera de servicios especializados y cada centro es referente

este es un buen modelo que ha funcionado a nuestro entender bien y es muy bien valorado estamos hablando señorías de un modelo que viene pero con unas bases muy sólidas sin perjuicio obviamente de que pueda ser susceptible de mejora en algunos aspectos en este sentido en la comparecencia de la comisión de salud y consumo la propia gerente

entre los que estaba la captación de pacientes externos procedentes de compañías de seguros mutuas y

ya que esto como ustedes saben suponía el quince por ciento de los ingresos no podemos criticar por tanto que onkologikoa pretenda completar sus ingresos con otras actividades complementarias

claro está en el contenido del convenio que se ha suscrito con

en el partido popular consideramos que la posición de la integración

modelo y la situación de onkologikoa no mejoraría

recursos especializados y profesionales con el objeto de dar

y también personas del departamento de sanidad con el objeto de reflexionar

oncológica para identificar posibles ámbitos de mejora

encaminadas a concretar dicha colaboración se identificaron esos ámbitos de mejora o posibles ámbitos de mejora y medidas

la integración de la atención oncológica la atención entre los dos centros el centro oncológico y el centro

y una utilización más óptima y eficiente de los recursos que disponen ambas instalaciones sin caer en duplicidades o evitando las duplicidades que pudieran haber existido

instituciones con titularidad diferente pero que comparten un mismo objetivo la colaboración pública privada es positiva

y eficiencia no alcanzo a entender las manías persecutorias que tienen algunos de ustedes con este asunto

algunos no la plantearan cuando tenían responsabilidades de gobierno y responsabilidades de gobierno precisamente hace muy poquito

concierto firmado el diecinueve de diciembre de dos mil trece y la financiación recogida en el mismo para la actividad concertada creemos que ha supuesto un paso importante

y afianzar una atención integral y de calidad la viabilidad del oncológico es competencia de la kutxa como propietaria

y respeten el contenido del concierto suscrito onkologikoaren bideragarritasuna kutxari dagokio

behar diren erabakiak hartu behar ditu así en su día kutxa decidió realizar una importante inversión dirigida

un centro de excelencia para tratar a las personas

creemos que sinceramente no es acertado lanzar continuamente sobras de sospechas sobre una institución que funciona que está haciendo un esfuerzo por mejorar su gestión

y seguir atendiendo los pacientes que se derivan de la red pública uste dugu gaur egungo

para ello es necesario garantizar una financiación suficiente y estable por parte del gobierno vasco

estas cantidades como no podía ser de otra forma se deben destinar al fin correspondiente que es la atención a los pacientes oncológicos que se derivan

la enmienda del partido popular recoge las ideas que acabo de plasmar en esta exposición alderdi popularraren zuzenketan aipatutako ideiak jasotzen dira en ese sentido planteamos que el gobierno vasco

los compromisos adquiridos y en especial el de mantener el apoyo económico necesario con una financiación suficiente y estable para garantizar que se preste un servicio de calidad integral y de referencia en el tratamiento investigación del cáncer a aquellos pacientes que se derivan

ser tratados en onkologikoa nuestra posición en relación al acuerdo del siete de marzo de dos mil trece creo que quedó muy clara y creo que también hoy la he intentado dejar de la misma forma clara y no estamos a favor de la integración de onkologikoa en la red de osakidetza en la red pública de osakidetza porque creemos que no es la solución y creemos que el modelo actual

configurado funciona y creemos que además una vez suscrito

en la estabilidad y en la habilidad futura de onkologikoa en ese sentido nos pronunciaremos en contra de los

que buscan reeditar dicho acuerdo y por otra parte en relación a la enmienda de eh bildu se quiere mantener el centro onkologikoa como centro monográfico de carácter público pero

de marzo de dos mil trece porque no nos habla nada de la posible integración

a los servicios que se prestan actualmente en el hospital donostia en cualquier caso también votaríamos en contra de esta enmienda y defenderíamos por ser creo que la más ajustada a los planteamientos que

entre el departamento de salud y la fundación onkologikoa para los próximos cinco años este concierto

y ha garantizado por lo tanto la supervivencia a la que usted aludía pero además este hecho posibilitó poder ir dando pasos para profundizar en la integración funcional entre el hospital universitario y onkologikoa

a la obra social de la fundación kutxa y que se sepa nadie la ha

es decir se están haciendo avances muy significativos para poder ofrecer una atención oncológica de calidad

a este concierto se ha proporcionado estabilidad a onkologikoa

plenamente integrada en el sistema de asistencia sanitaria

claramente cuál es el nivel de compromiso del departamento de salud en este tema es cierto

con los ingresos que se derivan del concierto pero también es cierto que además del departamento de salud la financiación

de la obra social de la fundación kutxa o es que es algo nuevo

corresponden a aseguradoras privadas o incluso particulares son tratados también en las instalaciones de onkologikoa

disminución de la actividad y en consecuencia la disminución de la facturación junto al incremento de los costes estructurales hizo que onkologikoa se encontrara ante la situación de mayor incertidumbre a la que se haya tenido que enfrentar a lo largo de su existencia sin embargo a pesar de la difícil situación económica

optó por mantener el concierto optó por garantizarle una estabilidad económica para los próximos años y poder profundizar en la integración funcional que en definitiva

a la persona que necesita atención oncológica azken finean hori baita garrantzitsua

nosotros no vamos a entrar a debatir sobre la forma en la que debe solucionar sus problemas financieros y cubrir ese déficit estructural

creemos que no corresponde a los grupos parlamentarios entrometernos en aspectos de mera gestión interna de los recursos del onkologikoa

que están sin utilizar si ven posibilidades de poder incrementar

si ven la oportunidad de incrementar ingresos que les van a permitir acometer inversiones en tecnología no es de sentido común que se busquen nuevas vías de financiación de su actividad

orbegozo este es un asunto que fue debatido hace veinte meses

no han cambiado siguen siendo los mismos y ya los expusimos en aquella ocasión no sé si es de izquierdas o de derechas pero upyd en este caso

roncal y lo que el grupo socialista propone a través de esa iniciativa defendemos efectivamente que el onkologikoa de san sebastián se integre para garantizar su propio futuro y el mejor servicio

al conjunto de la ciudadanía y también para impedir que puedan surgir duplicidades o ineficiencias y para que este centro siga teniendo carácter

en la oncología por todas estas razones votaré a favor de la iniciativa planteada por el grupo socialista es posible que en esta ocasión a diferencia de lo que ocurrió hace veinte meses esta iniciativa no salga adelante parece que no hay mayoría parlamentaria suficiente para ello pero en todo caso nosotros vamos a apoyarla

creo que han quedado expuestas perfectamente las posiciones de todos los grupos parlamentarios y yo solo tendría que decir que las alarmas

no tiene suficiente con el concierto firmado puesto que está buscando otros ingresos y además que no sean de tratamiento

ese es el problema porque no se puede dedicar un centro a la investigación a la docencia a la mejor asistencia posible a la prevención a la asistencia al tratamiento y a la rehabilitación

si tiene que ocuparse de buscarse alquileres entradas de otras empresas privadas para sostener el centro porque es verdad que estuvieron aquí

que su aspiración no era sostener el día a día del centro

quieren que el centro se sostenga por sus propios recursos y en todo caso cuando toque renovación o inversiones participar claro que todos sabemos que kutxabank tiene una deriva que no sabemos donde va a terminar no sabemos tampoco cuántos recursos va a haber

desde luego lo que sí hemos visto es que la fundación kutxa ha dejado de subvencionar ha dejado de sostener instituciones y centros

por lo tanto cuando veas las barbas de tu vecino pelar ya sabes segundo las razones que nos ha planteado

tengo que decirle que no convencen ni a las instituciones guipuzcoanas

ni tampoco a los trabajadores del centro los trabajadores del centro no consideran que tengan ni su presente ni su futuro garantizado

la posible actual comodidad porque no garantiza como ya hemos visto ni el presente en el futuro tercero tendría que decirle que la integración es un proceso evidentemente de la noche a la mañana no se puede absorber un centro

hay que mencionar que basurto es muy distinto basurto ha sido una fundación privada desde el primer minuto con patronos que sostenían el hospital

ni la presente ni la futura y qué pasó que las instituciones vizcaínas con la diputación a la cabeza asumieron asumieron dar seguridad al centro y su integración en la red pública

que asumió todas las deudas que tenía hasta ese momento el hospital de basurto y así pudo pasar limpio de deudas a

con la kutxa con la financiación de la kutxa para que asuma esta en un proceso de años o del tiempo que sea adecuado asumir las deudas

al departamento de salud por qué no por qué lo que es posible para los vizcaínos no es posible para los guipuzcoanos y esta pregunta se la haría también a la responsable del pp por qué la integración dice que no mejora qué pasa que la historia de basurto nos demuestra que la integración en la sanidad pública no mejora la situación del centro cualquiera que compare la situación de hoy de basurto con la que tenía hace veinte años se da cuenta de la enorme mejora que ha tenido la gran mejora por cierto no solo el centro en sí si no la atención sanitaria que presta a todos los bilbaínos porque para lo que se integra no es solo

es para que preste una atención sanitaria y un servicio sanitario mejor a la población la población de bilbao hoy está mucho mejor atendida que hace veinte años por qué porque el hospital de basurto está mejor dotado está bien equipado y tiene unos profesionales satisfechos por qué no puede pasar eso con el onkologiko díganme por qué

que diga que no va a mejorar con la integración es que las pruebas que tenemos es que los que han pasado han mejorado es que han mejorado todos

y respecto a los que dicen que podíamos haber hecho

no sé si en tres años y medio hércules podía haber hecho todos los trabajos que tenía encomendados

ez dauka sinesgarritasunik porque señora roncal ustedes gobernaron hasta hace dos años y si tantas bondades tiene la integración del onkologikoa en la red pública de osakidetza

hasta hace dos años y también gobernaron cuando era del señor freire consejero es decir ustedes

que el discurso que ustedes están manteniendo en relación a esta cuestión en esta legislatura y será por eso de que ahora están en la oposición no es nada creíble con las posiciones

responsabilidades de gobierno y no han planteado que esto se integre en la red pública de osakidetza ya le digo si tantas bondades tenía tendría entonces también y ustedes nada

y mire la viabilidad de onkologikoa en lo que

y a las derivación de los pacientes que se atienden de osakidetza

hace un año y aparece ahí la cuantía económica veintitrés millónes de euros y que ese

a los cinco años y así se garantiza la financiación del ochenta y cinco por ciento de la fundación onkologikoa pero mire es que además la que es propietaria de onkologikoa es kutxa

las decisiones pertinentes para garantizar la viabilidad de onkologikoa y kutxa

en donde están ustedes representados y ustedes no han planteado ninguna decisión en relación a lo que esta legislatura están planteando en esta

personas sentadas y no están haciendo ningún planteamiento ni se han planteado que se ponga a la venta

usted viene aquí hacer un discurso pero los órganos de representación

o incluso como le decía antes cuando han ostentado responsabilidades de gobierno no han tenido

semejante y tengo que decirle si se respeta el contenido del convenio suscrito en lo que es el contenido del convenio respeto a la derivación de pacientes de osakidetza a onkologikoa

ese concierto creo que estamos hablando de un buen modelo que ha funcionado

para la sociedad guipuzcoana y para el resto de los ciudadanos vascos y no solo de osakidetza sino también como se ha dicho aquí otras personas particulares

nosotros creemos que el modelo actual sin perjuicio de que pueda

y nosotros hemos pedido a este gobierno que se sigan haciendo esfuerzos en ese sentido esfuerzos en coordinar las dos estructuras aprovechar las dos estructuras los servicios punteros que tiene cada una

y sobre todo creo que tenemos que ser muy conscientes de que no hace muchos años

onkologikoa que no se puede desaprovechar y usted habla de las bondades que le expliquemos las bondades las bondades del sistema y el modelo que tenemos están ahí

plantear a través de algún estudio a través de un comité de expertos en el propio patronato donde tienen representantes cuáles son las bondades que ustedes

más bien electoral pero desde luego no se corresponde con los hechos y con las decisiones que se toman

guste o no guste la fundación kutxa es la propietaria

que no es kutxabank sino que es la fundación kutxa es la responsable de gestionar los recursos de los que dispone de buscar fuentes de financiación

y es la que mejor conoce sus recursos si existe infrautilización de espacios

dirijamos cómo tiene que ser la gestión económica de onkologikoa

de las dificultades que existen para llevar a cabo lo que propone el grupo socialista a través de esta iniciativa o incluso más allá de sus propias incoherencias porque efectivamente tal y como aquí se ha dicho cuando el grupo socialista gobernó

a mí me parece ciertamente curioso que el propio departamento de salud y el propio gobierno no consideren que la integración del oncológico

poca confianza en el servicio público de salud tiene poca confianza en el departamento de salud y tiene poca confianza en el gobierno es triste pero parece ser que es así y además hay precedentes que indican justo lo contrario porque este proceso de integración se ha llevado a cabo

como es el caso del hospital del alto deba o del hospital basurto esto hace años se llevó a cabo y el resultado ha sido positivo pero bueno en fin allá cada cual con

nuestros argumentos los hemos expresado los compartimos con el grupo socialista y en este caso votaremos a favor de su iniciativa gracias eskerrik asko maneiro jauna